está relacionado con la gasolina con el precio de la gasolina con esa preocupación permanente que la ciudadanía tiene desde hace muchos años en nuestro país la gasolina no es un producto más de consumo es un producto singular

el precio de la gasolina es determinante para la industria lo es para su desarrollo lo es para su recuperación también lo es y mucho

por lo tanto el precio de la gasolina es importante para la inmensa mayoría de los productos de consumo y por lo tanto también lo es para la calidad de vida de las personas para la calefacción la movilidad así como para otros usos

en el contexto económico actual es una necesidad económica y también es un acto de justicia social porque de él dependen oportunidades

y con ellas el empleo y la atención a quienes más sufren con la crisis aprovechar los instrumentos que tiene creados la política para ayudar a que esto suceda es una obligación que tenemos contraída con la ciudadanía y que hoy estamos ejerciendo

este parlamento con este debate puede y debe influir en este asunto instando al gobierno de españa a actuar este parlamento puede y debe llamar la atención y la acción

y perseguir prácticas concertadas prácticas que lo que hacen es perjudicar al consumidor este parlamento puede y debe orientar y ayudar a los consumidores para conocer y usar los precios

estos objetivos razonables y razonados son los que persigue esta iniciativa

de esta cámara algunos datos resultan muy ilustrativos en relación a de dónde venimos dónde estamos y dónde debiéramos estar en un futuro sobre el precio de este producto

a ciento catorce dólares solo hace unos meses en octubre hace menos meses todavía a ochenta y cuatro esta semana se ha pagado a cincuenta y siete habiendo llegado a estar en algún momento a cuarenta y siete en solo dos días de esta semana para que hubiera una

en torno al veinte por ciento del precio del barril ha bastado con un informe que aseguraba

la bajada se produjo cuando se conoció otro informe que iba en dirección contraria

de oferta y demanda son factores decisivos en el precio y es por ese peso de la política en este asunto del que estamos hablando por lo que la política debe intervenir en ayudar a la economía individual y colectiva en este gravoso y especulativo producto para la ciudadanía a fecha de hoy cuál va a ser la evolución del precio del petróleo es incierta tan incierta como cierta es la guerra entre productores por inundar el mercado de previsiones interesadas para que unas hablen de que el precio seguirá bajando y otras de que subirá

cómo nos enfrentamos a este problema de qué lado nos ponemos qué intereses protegemos y a quiénes defendemos

a la especulación queremos proteger el interés general de la economía y queremos defender a los consumidores

daré más datos el precio medio del barril de petróleo en dos mil doce fue de ciento diez dólares en dos mil once de ehun eta zazpi en bi mila zortzi de berrogeita bost

a treinta y seis estas enormes variaciones solo cuando son al alza son rápidamente reconocibles

como todo el mundo conoce el precio de la gasolina que paga el consumidor contiene el precio del petróleo el refinado y la transformación y un alto porcentaje de impuestos

este conglomerado de conceptos que repercuten en el precio de la gasolina con frecuencia se utilizan para justificar la lentitud y la tibieza con la que se trasladan las bajadas

como he señalado anteriormente el precio de la gasolina contiene un elevado porcentaje de impuestos por eso su reducción afecta directamente a la recaudación y por eso a veces se perciben resistencias y lentitud para intervenir desde la propia política

de barriles al día estamos hablando del consumo de un producto que afecta al interés general según un informe realizado recientemente mientras en un determinado periodo de tiempo el petróleo se ha rebajado en un veintidós por ciento las gasolineras han mejorado su beneficio en un cinco por ciento

del petróleo tres compañías se reparten casi todo el mercado compañías que son a la vez productores y refinadores compañías que controlan la red de distribución al por mayor y que también abastecen a las gasolineras imponiéndoles sus precios

la investigación a cepsa bp y a repsol con respecto

porque permanentemente estas compañías están bajo sospechas de prácticas concertadas señorías ayer había gasolinas que vendían el diesel ayer mismo a uno coma dieciséis euros y otras a cero coma noventa y ocho y cero coma noventa y nueve euros litro

muy amplios que hay márgenes en torno al veinte por ciento ahora mismo y por lo tanto que hay razones para que se conozcan y se influyan a que se extiendan a más expendedores hace muy poco tiempo se llegó a pagar el litro

por qué hoy que se paga el barril a menos de cincuenta y siete dólares

que use la política como instrumento de defensa del interés colectivo del interés de la economía en general como medio de desarrollo de nuestras oportunidades y calidad de vida y en defensa del interés del consumidor la política puede y debe poner en defensa de la ciudadanía vasca sus instrumentos

y que sufragan con sus impuestos el gobierno vasco la autoridad vasca de la competencia son algunos de ellos en nuestra iniciativa instamos al gobierno de españa a que tome medidas para que se respete la libre competencia a que se limite la intervención de los operadores

comerciales entre operadores a que se fomente más la competencia entre estaciones de servicio en nuestra iniciativa instamos al gobierno vasco a que tome medidas de transparencia a través del instituto vasco de consumo para defender a los consumidores en las funciones asumidas por kontsumobide

se establece la de promover y llevar a cabo los estudios necesarios y de evolución de las dinámicas de consumo con el fin

de fijar los instrumentos y los procedimientos que permitan a las personas consumidoras y usuarias elegir mejor los productos y servicios más adecuados a sus necesidades y exigencias y es para esta iniciativa con este conjunto de propuestas

de esta cámara esta iniciativa ha contado con una enmienda del grupo nacionalista esa enmienda del grupo nacionalista ha dado pie a una enmienda transaccional que acabamos de presentar en ese enmienda de se hace una síntesis de los dos planteamientos por un lado pedir la intervención de los gobiernos pedir la intervención de los tribunales o de la autoridad de la competencia

concertadas y para que se mejore el precio en defensa del consumidor y por otro lado instar a estos mecanismos que tenemos de defensa del consumidor

y de ayuda a la ciudadanía para que pueda elegir encontrar y también influir en que cada vez haya una proliferación mayor de precios más baratos de los que actualmente existen por lo tanto al conjunto de los grupos que no han presentado iniciativa

su apoyo también para esta enmienda transaccional y para que este parlamento se pronuncie en el sentido que así
se ha redactado muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

es el incienso de la civilización bajemos rápido vamos a ser más pragmáticos

aún siendo estratégico para la economía de un país en europa funciona a medias entre un sector regulado

utilizan el consumo de estos productos como mecanismo muy sencillo y barato de recaudar impuestos

son impuestos si el descenso del precio medio de la gasolina en euskadi entre enero de dos mil catorce y enero de dos mil quince ha sido del veinte por ciento

más del cincuenta por ciento del precio es decir la gasolina no sigue miméticamente el precio del petróleo aparte de que lo hace con retraso temporal aunque siendo riguroso hay que considerar que por un lado como ya he dicho el cincuenta por ciento del precio son impuestos

además de que resulta necesario conocer la relación euro dólar la cual por cierto ha sufrido en la época que va desde octubre fecha en la que se presentó esta pnl hasta hoy una variación del doce por ciento o sea hoy a europa

no obstante tampoco vamos a quejarnos pues si el estado español es el quinto país

de la ue antes de impuestos ocupa el diecisiete en el precio final por ejemplo a finales del dos mil catorce el precio de la gasolina del estado era un doce por ciento más barata

si vamos reduciendo el marco comparativo de precios entre provincias del estado

el precio osciló entre la más cara en huesca y la más barata en jaén con un diferencial de precio medio del cuatro coma siete por ciento

entre enero de dos mil catorce y el dos mil quince el precio medio en gipuzkoa

mientras que el diferencial de precio medio entre los tres territorios no supera el dos por ciento ahora si vamos reduciendo el marco comparativo y nos venimos aquí en un radio de cinco kilómetros del sitio en el que estamos tenemos hoy

y uno coma ciento ochenta y nueve es decir tenemos para un depósito de sesenta litros un diferencial de nueve coma ochenta y cuatro euros es decir de dieciséis por ciento o de cuatro cañas

aparte de preguntarse alguien ajeno a qué se debe tanto precio en un debate supuestamente político

su precio que el petróleo se produce una dispersión de precios entre países comunidades territorios y barrios

sobre cómo se conforman con certeza sobre todo si descubrimos que el diferencial es menor entre la media de los países europeos que en el entorno de una sola ciudad

sobre cuál es la razón real de hablar de precios de la gasolina en un foro como este

no lo negaré pero hablar de cómo se conforma el precio de la gasolina

pues no sé puede ser política pero a mí me parece un pelín forzado

resulta de importancia estratégica para la economía de un país

y se supone que existe un entramado diversificado de empresas que deberían garantizar

podría entenderse como de gran calado político un debate en el que dada la importancia estratégica

alguien pretendiese legítimamente proponer un control directo del estado sobre su producción transformación transporte y comercialización pero lo que

se ofrezca una mayor liberalización efectiva del mercado y por tanto ello pueda llevar a un cierto mayor descenso de los precios está bien

nuestra enmienda lo único que pretendía era solamente tratar de lograr una mayor libertad

en la transacción dice que nos hemos puesto de acuerdo en esa porque hay que buscar

lo que parece una falta de competencia suficiente para que el mercado

parece que habiendo pocos operadores comerciales el régimen de oligopolio sí está favoreciendo ciertas actitudes de control de mercados y precios no obstante

de que los impuestos públicos son los mismos para todos los operadores y que además componen el cincuenta por ciento del precio

como he intentado explicar en la primera fase de esta intervención que no parece que ese monopolio de precios se produzca con tanta intensidad pues no hay más que observar la elevada diversidad de precios tanto que en un entorno de cinco kilómetros del punto en que estamos hay un diferencial del dieciséis por ciento diferencial que es muy difícil encontrar en cualquier otro producto en un radio tan pequeño aunque tampoco muy bien lo deben de hacer

entre otras cosas porque forzaban a algunas gasolineras a mantener determinados precios y la segunda parte de la proposición del señor prieto

los datos comparativos semanales del costo de la gasolina en todas las gasolineras y como esto va ocurriendo con cierta frecuencia

los precios de la gasolina en el universo gasolinero vasco pero también

aparte de que es enormemente fácil encontrarlo en cualquier página web o aplicación de móvil

sé que mola mucho kontsumobide pero no se trata de un organismo para llenar su trabajo y su página de todos los datos de precios de cualquier producto que se le ocurra a este parlamento no se puede ofrecer una comparativa de los precios del jamón de york de los yogures con bífidus para que el consumidor elija

más en el caso de la gasolina en que insisto hay cientos de páginas web y aplicaciones sé que la gasolina es más importante y más estratégica que el jamón de york pero por ejemplo

nadie todavía se le ha ocurrido aunque si yo lo digo es probable que pueda ocurrir

parece más correcto y es a lo que hemos llegado en la transacción que kontsumobide publicite o de

en toda la parafernalia de posibilidades que tienen el instituto vasco de consumo para publicitar

minimizar lo que se debate pero creo que hay que empezar a contextualizar cada cosa y hacer política no es solo hablar de lo que les interesa a los ciudadanos que para eso están las tertulias

asuntos que trascienden de la capacidad política de este parlamento y del gobierno que sostenemos o criticamos significa que solo hay dos salidas o dejamos de hacer apelaciones a temas que no nos corresponden por resultar en términos generales brindis al sol

las abordemos debatamos y ofrezcamos soluciones eskerrik asko eskerrik asko tellería jauna

gracias señora presidenta buenos días consejeros señorías

fijar la posición en cuanto a la enmienda de transacción que se ha firmado por el grupo y el grupo nacionalistas vascos vamos a votar a favor porque creo que ha centrado más en aquellos ámbitos donde puede ser más eficaz sobre todo en el primer punto si me fijo en la iniciativa que presentó en la justificación de la iniciativa que presentó el señor prieto breve donde venía a decir que la tendencia ha sido la de mantener los precios ante la bajada del precio del petróleo y yo le voy a decir que su iniciativa está firmada el veintitrés de octubre de dos mil catorce presentada

y nos basamos en el último informe de la comisión nacional de los mercados y la competencia donde dice que el precio venta al público promedio de la gasolina disminuyó en diciembre de dos mil catorce un ocho coma nueve por ciento por sexto mes consecutivo el gasóleo disminuyó un ocho coma tres por ciento por cuarto mes consecutivo lo que le

presentó la iniciativa ya se producían descensos en el precio de la gasolina y en el precio del gasóleo probablemente no el que a todos nos hubiera gustado que fuera había descensos los precios medios de venta al público de los carburantes de automoción fueron en dos mil catorce inferiores a los del ejercicio dos mil trece un tres coma cuatro por ciento inferior para la gasolina noventa y cinco y un cuatro coma uno por ciento para el gasóleo ya se ha dicho aquí hay varios factores que intervienen en el precio de la gasolina está la cotización internacional la depreciación del euro tuvo alguna efecto en el precio del gasóleo y por ejemplo los precios antes de impuestos promedio disminuyeron un quince coma cuatro por ciento para la gasolina noventa y cinco y un doce coma ocho por ciento para el gasóleo

de la caída experimentada por su correspondiente cotización pero también como se ha dicho aquí están los impuestos autonómicos que de alguna manera

y aragón ya quitaron este impuesto autonómico a los carburantes cantabria lo ha quitado para dos mil quince

luego están los operadores y las estaciones de servicio cuáles son las más económicas las más baratas las estaciones de los

les siguen las estaciones de servicio independientes

con excepciones de servicio en también hay diferencia por ejempro bp oil tiene los precios más bajos en gasóleo a durante el dos mil catorce

en bp oil durante el primer semestre sin embargo es repsol quien en el segundo semestre tiene el precio más bajo también la situación de las estaciones no es lo mismo que un establecimiento

también varía el precio por lo tanto señor prieto usted presentó la iniciativa la gasolina como le decía llevaba ya tres meses reduciendo el precio nosotros lo que le queremos decir

a que el gobierno de españa haga haga le tengo que decir que la ley once de dos mil trece de veintiséis de julio de medidas

introdujo medidas para aumentar la competencia en el sector de la distribución al por menor de combustibles y carburantes facilitando la apertura de nuevas estaciones de servicio y limitando el poder de mercado

desde la entrada en vigor de esta ley hay trescientos diecisiete nuevas estaciones de servicio independientes de los grandes operadores que han introducido competencia

diferencias como le decía antes de entre seis y ocho céntimos por litro esta ley además establece otras medidas establece que las administraciones autonómicas deberán integrar en un procedimiento único y ante una única instancia la autorización para la apertura de nuevas estaciones de servicio amplía el tipo de suelos donde se puede instalar estaciones de servicios

o industriales con instalaciones de suministro de combustible se limitan las condiciones de los

a un año y no podrán incluir cláusulas que directa o indirectamente fijen o recomienden el precio de venta al público del combustible y como ya se ha mencionado de alguna manera la comisión nacional de mercados y la competencia ha sancionado y se ha publicado

no uno millón de euros dos coma cinco millónes de euros y a bp oil

por fijar precios a las gasolineras por lo tanto sí que existen medidas para hacer control pero en cualquier caso el gobierno
de españa sigue intentando isiltasuna mesedez ajustar lo que son las ganancias o los
de los operadores también se fija como máximo un treinta por ciento de cuota de mercado para los operadores instalados en una provincia por cierto

ha presentado en el congreso de los diputados una modificación de algunos artículos de algunas leyes que donde decía treinta se baja a veinticinco creo que eso va a ser fácilmente negociable

una reforma de la ley de hidrocarburos para ajustar

parámetros como le decía antes para que los márgenes de los operadores no representen no sean abusivos para los consumidores por lo tanto

tampoco está satisfecho el gobierno de españa y por eso presentó la modificación de la ley de hidrocarburos espero que el gobierno de mariano rajoy cuente con el apoyo del grupo socialistas en el congreso para modificar

y que su labor para que esto sea así va a ser importante eskerrik asko lópez de ocariz andrea eh bildu taldearen ordezkaria den maeztu

para agradecer a todos los grupos el apoyo a la enmienda transaccional eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak ez du hitzik hartu behar

lehendakari consejeros esta proposición

que trae mi grupo pretende una vez más hacer una defensa de la renta de garantía de ingresos la renta de garantía de ingresos es un valor de la sociedad vasca

seguir trabajando defendiendo como una seña de identidad que nos caracteriza ahora bien precisamente para que la renta de garantía de ingresos tenga un apoyo unánime y sea entendido como una política social

por la solidaridad de todos debe llegar a las personas que de verdad

en este momento en euskadi están sucediendo a la vez dos cosas por un lado estamos viendo todos los días situaciones de

que no deberían cobrarlas pero esto no es mi opinión ni siquiera es la opinión del grupo popular es la opinión del gobierno vasco y es la opinión del anterior consejero de políticas sociales supongo que también del actual hay datos que ponen de manifiesto que hoy con la solidaridad de los vascos no se está llegando a las personas que de verdad lo necesitan sino que hay quienes saben conseguir acercarse a la renta de garantía de ingresos para de forma fraudulenta y abusiva

a la vez en euskadi se están produciendo situaciones de personas que sí tienen

de trabajo de esfuerzo y que pasan por situaciones complicadas a las que el sistema a las que nuestro sistema les dice para ti no hay o para ti

y eso sucede todos los días de forma dramática en las oficinas de lanbide por tanto en euskadi a la vez que estáis permitiendo que haya personas que cobren las ayudas sociales sin merecérselo o directamente haciendo fraude y abusos

colgados a personas que tienen la necesidad que tienen el derecho y para los que la respuesta es para ti no vamos a los datos concretos en relación a lo primero se ha debatido mucho respecto a las respuestas que el gobierno vasco

ha proporcionado en relación a los pagos indebidos y al fraude como se mezcla lo que hace mal lanbide

no hay abuso en la rgi lo que hay es una mal labor de lanbide

y hay que decir lanbide no lo hace todo bien eso es una labor pendiente y hay algunos especialistas en el fraude y en los abusos algunos con la actual norma y otros por la actual norma

de los millónes de euros a los que el gobierno vasco hace referencia cuando habla de pagos indebidos y fraude voy a coger solo lo que todos estamos de acuerdo que es puro fraude

uno perceptores que ocultan datos y cometen actuaciones fraudulentas esto es en respuesta parlamentaria

perceptores que no acreditan su situación económica real que mienten con los datos un millón ciento noventa y nueve mil euros perceptores que dicen que hacen una cosa

es decir aplican la prestación a otra finalidad dato oficial

perceptores que no comunican hechos que dan lugar a suspender la prestación ocultan esa realidad trece millónes

hace falta continuar son cifras reales son las cifras de lanbide son los datos públicos de personas que se ponen por delante de otras en la cola de lanbide

tener derecho a ella eso lo estamos permitiendo por otro lado nos encontramos con situaciones dramáticas y hoy traemos una de ellas aquí una de las que consiste en decir sí y sí a estas personas para la rgi en concreto

por el escaso nivel de prestaciones en las pensiones que el sistema general tiene

seguir incrementando las pensiones más aquí en euskadi que nos gusta a todos

que tenemos un sistema de autogobierno propio y que tenemos competencias propias y que nos gusta ejercerlas y por eso

con gran acierto hay un sistema de complemento de las pensiones más bajas por eso

y queremos ejercer ese derecho qué sucede ahora en la actualidad que a pesar de esa situación hay pensionistas yo tengo el dato de los que sucede en mi tierra en vitoria

en mi tierra en vitoria el dieciocho por ciento de las personas mayores que viven con una pensión con esa pensión sustentan a toda la

a toda a toda a veces es un hijo una hija que no llega

eso sucede en euskadi y a esas personas no les llega con la pensión y con los actuales complementos de pensiones

saben por qué por que cuando te acercas a muchos de los perceptores en la oficina de lanbide

que es un deber que tenemos todos te dicen yo no

de febrero porque prefiero con mi pensión ayudar a mi nieto o dar de comer a mi hijo

para permitir que haya lo que vemos todos los días en el periódico o para ayudar a las personas que de verdad lo necesitan tenemos un sistema de competencias propias tenemos un sistema de rgi que permite aquí en euskadi complementar

con pensiones más bajas sí o no sí verdad pues ayudémosle señor consejero es la cuenta de la vieja yo no comparto la opinión de su grupo

yo no comparto la opinión de que hay que subir los impuestos como ha dicho el pnv para pagar las políticas sociales también esto no lo comparto porque aquí en sus datos

ayudar a nuestros mayores a las personas que han currado cuarenta años y que ahora con su pensión están diciendo

señor consejero señores parlamentarios en las oficinas de lanbide todos los días hay quien sabe metérnosla doblada y reírse de todos los vascos a la cara

que hay algunas personas que saben cómo venir al país vasco y entre una cosa y la otra cobrar euros de rgi todos los meses eso sucede con el actual sistema

es racismo o llamar a las cosas por su nombre porque es llamar a las cosas por su nombre y creo que debemos estar menos preocupados

porque los problemas de la calle son otros son estos

en las ventanillas de lanbide que desgraciadamente son demasiadas personas de forma cotidiana miren la propuesta es muy sencilla en la

que es una señal de identidad y que yo defiendo como defiende mi grupo

lo está haciendo dinamarca lo está haciendo suecia lo está haciendo el reino unido lo está haciendo alemania para decir sí a la solidaridad pero sí a la solidaridad bien entendida

al que se lo ha ganado al que tiene un derecho al que demuestra que no le llega no podemos seguir teniendo un sistema de prestaciones en los que se dan datos oficiales

y quedarnos tan panchos es vergonzoso que permitáis

y a la vez impidáis a los pensionistas poder cobrar ochocientos

puede ser políticamente incorrecto pero es lo correcto en la política es hablar de los que nadie

ayuda sí abuso no pero qué es lo que no se entiende de esto

qué es lo que no se entiende cuando se está diciendo no se puede

y delinquir por la noche no se puede señor consejero no se puede y nuestro sistema lo permite ni se puede

hoy la verdad es que no teníamos ni idea de que esta proposición de ley iba a coincidir

casualidades de la vida primer día tenemos un asunto que es una pelota caliente que tiene usted en su despacho que se la han dejado más gorda y más caliente por cierto pero hoy

hoy con su grupo vamos a votar esta propuesta se trata de decir con el dinero que ya está contrastado en abusos y fraude

vamos a ayudar a nuestros mayores con seiscientos euros al año

cincuenta euros al mes ya sé que también se puede hacer vía decreto de pensiones en madrid cincuenta y quinientos para qué están nuestras competencias las queremos ejercer porque si no las queremos ejercer eliminamos el complemento de pensiones vía rgi a qué no

lo hacemos hoy tiene usted la prueba del algodón señor consejero es más de lo mismo

en unos minutos yo creo que la sensibilidad no entiende de siglas usted como lehendakari como el último de los parlamentarios yo soy el último de los parlamentarios tenemos la obligación de estar a pie de calle

yo lo hago y es durísimo encontrarse testimonios como los que he hecho referencia en esta cámara es imposible explicarle a una pensionista que tiene que hacer ese sacrificio porque lo hacen con el corazón porque les sale del alma con mi pensión tengo que mantener a los míos a pesar de haber estado trabajando cuarenta años ahora tengo que seguir

es la solidaridad que nos define a los vascos pero a esa señora a ese señor a ese pensionista no se le puede decir que a la vez estamos consintiendo lo que pasa en el periódico todos los días que el de al lado se puede llevar diez mil euros en rgi mensual

y cobrando que el de al lado puede llegar cumplir tres años de padrón

no puede ser no es un tema de siglas es un tema de corazón es un tema de sentimiento es un tema de solidaridad por eso entre sus filas entre las suyas entre las de estos señores entre las nuestras

yo me apunto a esto simplemente es ayudas sí abuso no espero

tener la ocasión de decírselo en esta primera sesión en el parlamento

usted ha llegado a esta cámara vestido en esta ocasión con pieles de cordero para presentar una iniciativa benéfica casi beatífica para que los jubilados con pensión más baja

el complemento que les corresponde a través de la renta de garantía de ingresos y dicho así y si no hubiera historia casi me dan ganas de pedir su canonización créame hasta que uno recuerda que el partido que propone ahora complementar la pensión aquí en euskadi es el mismo que la recorta en toda españa el mismo y es el mismo que se niega a aprobar medidas para eliminar la pobreza energética

el mismo partido y que el parlamentario que trae aquí la iniciativa como alcalde de vitoria gasteiz y con el único fin

ha puesto demagógicamente en entredicho la renta de garantía de ingresos que aquí formalmente dice defender y ha creado

para que le haga la campaña tratando de presentar este colchón de seguridad para los más desfavorecidos como un foco de fraude que casi dejaría en mantillas al señor bárcenas y a los pobres defraudadores pillados por la lista falciani en suiza y otros paraísos fiscales azuzando los más bajos instintos que es lo más negro de todo lo que usted ha hecho al sugerir que las ayudas que no llegan a los de casa

los de fuera ahora ya no dice usted eso está en otra fase de la campaña

queriendo hacer ver que su único objetivo era corregir los supuestos abusos y disfunciones de la percepción de la renta de garantía cuando está grabado y recogido que abrió su campaña acusando explícitamente a marroquíes y argelinos residentes en vitoria gasteiz de querer vivir sin trabajar entre comillas porque sus frases exactas como si sobraran las ofertas de trabajo en una euskadi con ciento setenta mil parados pretendiendo en definitiva a unos pobres nacidos fuera contra otros pobres

eso es lo triste de su campaña y en ese juego señor maroto no vamos a entrar los socialistas por el contrario vamos a poner todo nuestro empeño en denunciarlo y en combatirlo porque no se puede primero abrir la caja de los truenos y sembrar el odio al diferente

y decir que todo se hace por el bien de todos una cosa es mejorar el sistema de la rgi perfeccionar su gestión y cerrar

el único que pone los zapatos en la calle señor maroto nosotros también andamos por calle

y la gente evidentemente quiere que se mejoren los errores y que se subsanen las deficiencias por eso en el segundo punto de nuestra enmienda

como los pensionistas o los trabajadores en precario o las familias numerosas o las monoparentales que están ahora mismo excluidas en muchos casos puedan también entrar

en la sociedad y para provocar enfrentamientos entre unos ciudadanos y otros con el único propósito señor maroto es que es muy evidente

de recoger votos es decir una fórmula ensayada por desgracia en muchos sitios

que estamos viendo en muchos países europeos porque es verdad que en holanda o en dinamarca o en noruega se están poniendo en marcha modificaciones pero no se ha hecho previamente una campaña de criminalización del diferente como usted ha montado aquí desde el minuto uno

las políticas sociales a las nuevas situaciones pero con el objetivo de defender un instrumento básico de cohesión y solidaridad social este es el espíritu

la red de solidaridad que entre todos hemos construido para tratar de evitar la exclusión de las personas que han sido zarandeadas por la vida

y al mismo tiempo reafirmar la disposición a introducir todas las medidas que sean necesarias para luchar contra los abusos de forma que estas lleguen de verdad a quienes de verdad las necesitan y en esa parte coincido con usted

y en este punto nos gustaría también porque aquí hay más de un actor nos gustaría que el gobierno vasco también hiciera sus deberes porque mientras por un lado el señor aburto salía

por el otro no dejaba de alimentar los bulos del pp con actuaciones como el envío masivo de cartas de reclamación de cantidades que él mismo había abonado indebidamente o no atajando con cifras reales la entidad real de los abusos que se cometen o dilatando

que a estas alturas sigue sin contar con una relación de puestos de trabajo y por lo tanto el gobierno también aquí tiene su responsabilidad nosotros queremos un gobierno que no sea un mero notario

queremos un gobierno que actúe que haga cosas y aprovecho que está entre nosotros el nuevo consejero de empleo vivienda y políticas sociales para darle la bienvenida

que le hinque el diente a los múltiplos asuntos que su antecesor le dejó crudos en su salto a la candidatura

desde la lucha efectiva contra el desempleo al diálogo social pasando por la política de vivienda o la armonización de los servicios sociales en toda la comunidad autónoma objetivo que está sin conseguir en este momento y por supuesto el asunto que nos ocupa

como la renta de garantía de ingresos para atender las situaciones de necesidad que no estaban contempladas en su origen pero como hemos señalado esto que es muy importante tenemos que abordarlo con el mismo espíritu que lo pusimos en marcha y no con el ánimo que se transparenta por desgracia porque lo suyo es una iniciativa tramposa señor maroto

en esta cámara una cosa es lo que usted empezó a decir en la calle

a la opinión pública para decir lo que usted dice primero tiene que ser creíble y usted

buenos días puesto que al señor maroto parece ser que le gusta hablar claro hablemos también hoy de manera clara y diáfana para que todos podamos entendernos usted señor maroto es la demagogia el populismo

convertidas todas ellas en parlamentario vasco aunque ciertamente no ejerza como tal y su actitud suponga un insulto a la política decente

ese es su discurso una desvergüenza política populismo barato eso es lo que es habla el señor maroto en la justificación de su iniciativa

y señala que es un principio de nuestra sociedad y de cualquier sistema democrático sin embargo convendría señalarle al señor maroto que a los hechos debemos remitirnos

y protagonista voluntario durante los últimos tiempos de uno de los mayores ataques habidos a las ideas de solidaridad y de igualdad al haber fomentado

la estigmatización de determinados colectivos de inmigrantes con el único objetivo de lograr adicional de votos eso es lo único que a usted le mueve en su actividad política tratar de hacer demagogia para lograr un puñado de votos los problemas de la sociedad a usted

en absoluto nada su único propósito es hacer demagogia para conseguir un puñado de votos ni la solidaridad ni la igualdad se fomentan

semejantes es justo lo contrario con sus afirmaciones y desde algunos de sus compañeros se ha puesto en cuestión el solidario sistema vasco de protección social

habla usted en la justificación de su iniciativa de reparto de la riqueza y de lucha contra la exclusión social y debo reiterarle

ni reparto de la riqueza ni lucha contra la exclusión social y en lo que se refiere al sistema vasco de protección social solo demagogia exageración exabrupto manipulación de datos falta de rigor y populismo

un mejor destino de los recursos públicos y de luchar contra las bolsas de fraude y los abusos que actualmente se producen en la rgi hoy también ha hablado de fraude prácticamente no ha hablado de otra cosa sin proponer eso sí ninguna medida concreta de lucha contra el fraude por otro lado señor maroto

fraude mayor ni abuso más repugnante que la corrupción política imperante ahora mismo en el conjunto de españa mucha de la cual ha sido protagonizada por el partido popular bankia caja madrid la gürtel los sobresueldos

bárcenas la muy posible financiación ilegal del partido popular las tarjetas opacas el escándalo que evidenció la operación y otros muchos casos de corrupción política que han arruinado y llevado directa o indirectamente

a la pobreza la ruina y la exclusión social un estudio recientemente publicado hablaba de que el coste de la corrupción política en españa

millónes de euros cuarenta mil millónes de euros

millónes de euros el coste de la corrupción política existente en españa

político su partido político no otro partido político el suyo tiene tiempo en la justificación de su iniciativa para recordar la situación dramática que viven

el problema es que olvida citar a los verdaderos responsables los responsables son los corruptos y los recortadores sociales y en concreto el gobierno de españa que en lugar de atender prioritariamente a los ciudadanos más indefensos optó por dejarlos en la cuneta

a su suerte y obviamente quienes decidieron recortar las pensiones congelarlas o no incrementarlas lo suficiente quienes derrocharon millónes de euros

absolutamente innecesaria quienes permitieron el fraude

en definitiva quienes nos han gobernado y nos gobiernan desde el gobierno de españa máximo responsable de las pensiones que cobran

deberíamos prioritariamente instarle señor maroto nosotros también creemos que nuestros mayores o los mayores merecen pensiones mejores

y demagógica y profundamente tramposa porque intenta trasladar la idea de que los mayores tienen pensiones bajas por culpa de los inmigrantes en las ayudas sociales protagonizado mayoritariamente según usted por inmigrantes esto mismo lo decía usted

seis meses hace dos días decía usted aquello de basta ya de pagar la nómina a los que delinquen

vamos a ayudar a nuestros mayores olvidando por cierto que muchos de los que han delinquido en españa durante los últimos tiempos pertenecían al partido popular esos son los verdaderos delincuentes que han existido y existen en españa muchas de las personas que desde el gobierno del pp o desde el partido popular

adquirido dinero público del conjunto de la ciudadanía arruinando a la mayor parte de la sociedad señor maroto es muy improbable

relativa a la renta de garantía de ingresos o a las ayudas de emergencia social

absolutamente irresponsables en relación al fraude en las ayudas sociales

a los que acusó de cono querer trabajar acusó a argelinos y marroquíes de no querer trabajar

y afirmó que algunas nacionalidades viven de las ayudas sociales y no tienen

actuaran del mismo modo además ustedes hablaron de inmigración masiva y de colonias enteras de inmigrantes que cobran las ayudas

de protección social algo que por cierto ni es cierto ni sería fraude desde entonces el partido popular vasco esa campaña absolutamente infumable sin otro propósito como decía antes que conseguir un puñado adicional de votos es lo único que les mueve

a qué es lo que pretende el partido popular vasco seguro que más de uno

en fin cada uno tendrá su opinión pero yo cada vez estoy más convencido de una cosa ustedes hablan de estas cosas y hablan del modo en que hablan de estas cosas únicamente porque no tienen un proyecto creíble ni para euskadi ni para españa porque no pueden hablar

intentan tapar sus casos de corrupción política en todo caso el resultado es conocido más desconfianza hacía los emigrantes y más división ciudadana

ha conseguido señor maroto más enfrentamiento ciudadano

y la estigmatización de los emigrantes ese es su principal logro se puede usted

por ese logro conseguido en fin a mí ciertamente me daría vergüenza y como ya dije hace tres meses todo representante político lo que debería hacer es impulsar

y la cohesión social no el enfrentamiento o la discordia en fin a partir de ahí presenta una propuesta que nosotros consideramos que es tramposa y absolutamente demagógica el partido que ha congelado las pensiones

y ha implantado el repago farmacéutico el partido político que ha gobernado a golpe de recorte social

innumerables casos de corrupción política intenta plantearnos una iniciativa en forma de parche con el propósito supuestamente de que de esa forma miles de ciudadanos vascos

es algo absolutamente demagógico y populista que desde luego nosotros no vamos a apoyar en absoluto vamos a votar favorablemente

creo que es también clara proponemos instar al gobierno vasco a fortalecer el sistema vasco de protección social de modo que puedan llegar los recursos públicos

para salir de la situación en la que se encuentran no solamente vamos a votar a favor de nuestra iniciativa de nuestra enmienda también vamos a apoyar

por el grupo socialista en fin señor maroto es posible que usted vuelva nuevamente en los próximos días en las próximas semanas a plantear debates

hágaselo mirar y reflexione si realmente y en concreto la política vasca merece de verdad representantes que enarbolen ese tipo de recursos o de discursos tan absolutamente demagógicos

porque la verdad no está usted solucionando ningún problema sino que está multiplicando los problemas

y pura antipolítica eskerrik asko maneiro jauna

behar dela diozuenean es necesario ampliar el número de perceptores

ampliando los supuestos o las cuantías de la misma garantizando que las prestaciones sociales lleguen a las personas que de verdad lo necesitan

eskatzen diet horregatik ppren izenean pentsiodun guztiei hace falta tener poca vergüenza para hablar desde las filas del partido popular de la situación dramática de las y los pensionistas y erigirse aquí

en su defensor imaginarle a usted defendiendo a los pensionistas es como imaginar a su amigo bárcenas luchando contra el fraude es un oxímoron

y de hacer discursos que incendian la convivencia ciudadana ya vale

cuando el señor maroto mira a quienes malviven con las miserables pensiones que decide su partido popular no ve personas solo ve votos si al partido popular le preocupara de verdad su situación nos estaríamos ahorrando este debate

estas personas le dan igual simplemente nos viene hoy con esta propuesta porque

de cara a las elecciones usted en su discurso se ha dirigido no a los pensionistas y a las pensionistas se ha dirigido a los jubilados y jubiladas no habla de los demás perceptores y perceptoras de la rgi como por ejemplo

por qué está claro porque los y las jubilados votan y los menores

no lo hace solo por eso lisa y llanamente electoralismo barato desvergonzado puro y duro hay que tener valor

él es el principal impulsor y mentor y cuyo objetivo

en euskadi para promover una iniciativa legislativa popular que modifique

los aspectos de la normativa en vigor que quiere modificar el partido popular con el señor maroto a la cabeza no son para ampliar los supuestos o la cobertura de las ayudas todo lo contrario están impulsando la recogida de firmas para presentar una ilp restrictiva

los requisitos de acceso a las ayudas sociales pretenden dejar fuera de cobertura a muchas de las personas que actualmente tienen derecho a las mismas beraz

eta blanco andreak ere holakoak aipatu ditu la solidaridad es un principio de nuestra sociedad y de cualquier sistema democrático las administraciones están obligadas a desarrollar todas aquellas herramientas

y de lograr unos sistemas de prestaciones sociales que contribuyan a evitar situaciones de exclusión social y a ayudar a todas aquellas personas que necesitan de una cobertura social

apustu hori aspaldi egina dugulako euskadin con la solidaridad de la sociedad

dotarnos de un sistema de protección social puntero tanto en el estado como en europa que ha permitido a muchas personas y familias no caer en la exclusión social

mejorarlo en la medidade lo posible compartimos que las administraciones públicas deben desarrollar todas las herramientas necesarias para contribuir

tendentes a evitar situaciones de exclusión social como recogen ustedes en la justificación de su iniciativa todas todas las administraciones públicas

y herramientas en euskadi llevamos trabajando en esa senda hace más de veinticinco años y por eso contamos con un sistema de protección social que se pone

pueden decir lo mismo todas las administraciones del estado señor maroto qué medidas concretas han tomado los representantes del partido popular

cuáles son las cantidades destinadas a la exclusión social por habitante en cada comunidad autónoma le voy a dar algunos datos del año dos mil trece en euskadi se destinan ciento cincuenta y dos coma sesenta y tres euros habitante para rgi y pcv en murcia gobernada por el partido popular

habitante a la renta de básica de inserción valencia también gobernada por ustedes

y la comunidad autónoma gobernada por el partido popular que destina más cantidad a este fin es cantabria

muy muy alejada de los ciento cincuenta y dos coma sesenta y tres de euskadi y esto es en resumen el cuarenta por ciento de la suma

le corresponde a euskadi euskadi aporta el cuarenta por ciento de todo lo que se destina a estas ayudas en el estado respecto a la iniciativa de hoy señor maroto cómo se puede tener la desfachatez de pedir el incremente

ustedes que se alternan en el gobierno de españa con el partido socialista

podrían y deberían incrementar las pensiones a los y las pensionistas pero han hecho todo lo contrario el poder adquisitivo de dicho colectivo es cada vez menor y no solo porque ayuden a sus familiares más cercanos como usted decía en su iniciativa sino porque las pensiones están estancadas desde hace muchísimo tiempo por lo tanto señor maroto hagan lo que tengan que hacer allí donde gobiernan apliquen todas esas herramientas que las administraciones han de poner en marcha para evitar la exclusión social de los pensionistas

háganlo prediquen con el ejemplo porque si no su mensaje es vacío hueco nada creíble es hora de que dejen claro qué pretenden hacer con la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social y las ayudas reguladas en la misma quieren endurecer los requisitos de acceso como defiende cuando se pone a la cabeza de la plataforma ayudas más justas o quiere ampliar la cobertura de las mismas el debate ha de ser serio

fuera de períodos electorales como hemos dicho en infinidad de ocasiones nos parece cuando menos poco responsable estar pidiendo una cosa un jueves y la contraria al jueves siguiente si creen que es necesario aborden la cuestión en su totalidad de forma sosegada fuera de titulares mediáticos y estoy segura

a mejorar el sistema alejados de demagogias y posturas meramente electoralistas le reto a que suban las pensiones a todos los y las pensionistas en el estado mediante normativa básica y en todas aquellas comunidades autónomas en las que tienen responsabilidades de gobierno

la forma para poderlo hacer también en euskadi a años luz está euskadi del resto de comunidades del estado por lo tanto creo que esta iniciativa

osotasunean kontutan edukita no las apoyaremos porque solo sirven para hacerle el caldo gordo al partido popular y a las posiciones defendidas por el señor maroto en particular

hace falta tener poca vergüenza para solicitar en euskadi lo que ustedes no cumplen allí donde gobiernan además euskadi ya favorece a los pensionistas complementando las míseras pensiones de viudedad y no contributivas hasta los setecientos euros

por lo tanto menos peticiones a los demás y actúen de acuerdo a lo que solicitan

lo único en lo que no debe convertirse este debate es en el y tú más en lo único en lo que no tiene que convertirse es en eso

en relación a unas declaraciones apoyadas en los datos que lanbide ha hecho públicos cuatro meses más tarde

lo anuncié en junio si se refiere a aquellas declaraciones en las que se apuntaba a esas dos nacionalidades marruecos y argelia donde se decía porque es un dato público que hasta el sesenta y cinco por ciento de esas personas no trabajan y cobran la rgi

si a usted no le hace reflexionar creo que tendría que mirárselo el dato medio de las personas que desgraciadamente en euskadi

y esa reflexión se ha hecho antes de mis declaraciones de junio también publicadas por el gobierno vasco

el observatorio ikuspegi donde dice

consideran que las personas en situación irregular

no lo dice el alcalde de vitoria lo dice la gente de la calle el sesenta y cinco por ciento

yo lo comparto sabe por qué porque lanbide que es el servicio vasco de empleo no puede emplear

y esto mi madre o la suya o el vecino de al lado lo que entiende es cómo o sea que entonces esto es

para toda la vida eso no lo entiende nadie y eso lo respalda

qué crispa en nuestro país que haya un periodista que tenga las santas narices

o que haya un político que es corrupto qué crispa en este país que haya un alcalde que se atreva a decir aquí hay fraude o que haya fraude

crispa el político corrupto crispa un sistema que permite el fraude

miren hay una cosa en la que efectivamente ustedes los del partido socialista son iguales que los del partido nacionalista vasco

en un estudio supongo que con la máxima credibilidad publicado en un medio de comunicación se hablaba del porcentaje de personas que compartían lo que estoy diciendo

el ochenta y nueve por ciento esta misma cifra el ochenta y nueve por ciento de las personas que habían confiado en el partido socialista y el ochenta y nueve por ciento de las personas que habían confiado en el pnv decían como digo yo que hay que introducir medidas de control para evitar todo esto

cómo que y porque usted es del partido socialista y el señor consejero

que están dando la espalda a mucha gente que hasta ahora había confiado en ustedes es tal cual ahora me sorprende mucho

no sé si lo que quería decir con esto de la piel de cordero que no es de cordero es

me ha hecho mucha gracia porque me ha permitido en este segundo mirar también en la tableta el porcentaje de personas esas

esas que dicen que votarían a podemos y el ochenta y siete por ciento de las que contestaban esa encuesta también

más control más solidaridad menos abusos qué es lo que no se entiende de todo esto qué es lo que no se entiende hay una situación

pero de dónde creen ustedes que han salido los datos de padrón que han permitido la denuncia

al mes del ayuntamiento de vitoria los he dado yo en colaboración con la ertzantza pero de dónde cree que sale esa trama y cómo se ha conseguido evitar

pero cómo que qué es lo que hacemos no hacemos otra cosa que hacer esto y termino con una reflexión

una reflexión que trata de ser amable para con el consejero le decía antes

hoy era su primer día como el primer día en la escuela de un niño hoy era la prueba del algodón del consejero hoy

hay muchos pensionistas que se estarán preguntando bueno y qué van a hacer me van a ayudar

yo que tengo una pensión con la que tengo que tirar para que llegue para toda la familia

hoy era su prueba del algodón ustedes van a decir que no van a decir que no se ayuda a los jubilados con pensiones más bajas señor consejero

prueba no superada yo les digo no se quejen después de que los ciudadanos perciban este parlamento y a ustedes como alejados de la política

de lo que preocupa a mucha gente la gente que no grita en la calle ahí fuera la gente que está en su casa sufriendo y además

por problemas como los que hemos hablado hoy aquí y mientras tanto ustedes

mire san javier usted no es el único preocupado por la situación de los desfavorecidos no como le he dicho antes que valía la pena canonizarle

como usted está muy preocupado por la situación de mucha gente y por el fraude

a ustedes les parece estupendamente bien que haya fraude y eso es trampa señor maroto es usted un tramposo desde el principio nosotros tenemos tanta preocupación o más que usted por solucionar estos problemas y se lo he dicho en mi intervención nosotros proponemos en nuestra enmienda los cambios normativos necesarios para que determinada gente no solo los pensionistas

y el colectivo que decía la señora blanco y aquellos menores de edad que se encuentran en situación de desamparo

electoral y yo no he usado el tú más para nada usted ha empezado aquí a soltar basurilla pero usted menos usted es el menos indicado para dar a nadie en este parlamento lecciones de lucha social y de lucha contra el fraude el menos porque lo hace con intenciones torticeras y además es que perdóname que le diga se le nota mucho que lo hace de esa manera

los pensionistas con baja pensión y visto que concede usted derechos no en función de la condición humana

de poner en marcha un sistema para que aquellos ciudadanos y había muchos

pudiesen tener también derecho y acceso a unos ingresos mínimos con las pensiones no contributivas porque su discurso señor maroto además de insolidario

las pensiones futuras porque excluye de su interés a quienes no cotizan y con unas tasas de paro como las que tenemos

como la que hay es bastante complicado que los que hoy están en la población activa pueda garantizar si quiera el pago de las actuales pensiones y mucho menos de las futuras por eso usted hace una selección de votantes y su selección ha concluido en que el es el colectivo de pensionistas con baja pensión objetivo electoral no objetivo social pero nosotros planteamos seleccionar a todos los ciudadanos que tengan problemas y que necesiten solidaridad que no es lo mismo que usted plantea usted selecciona y por lo tanto excluye a determinados colectivos que no le interesan electoralmente

a los ciudadanos de este país a muchos a volver a casa de sus abuelos proponemos que ningún ciudadano quede excluido

una utilización partidista de la protección social se propone por nuestra parte solidaridad y refuerzo como por cierto ya ratificó este parlamento

como hace usted permanentemente nosotros proponemos reformas que no excluyan a quienes hoy todavía están excluidos

como hoy ha hecho usted aquí nosotros proponemos que desde el gobierno se aporten ya los fondos de las ayudas de emergencia social

es el consejero de políticas sociales que se ponga a la tarea porque hay mucho tajo por delante eskerrik asko pastor jauna

presidenta señor maroto hechos no palabras cuáles son los hechos del partido popular cuáles son las actuaciones del partido popular cuáles son las políticas

pues bien se resumen perfectamente recortes sociales recortes de derechos políticas contra los ciudadanos que se encuentran en peor situación negativa a impulsar políticas y medidas concretas contra los desahucios recortes en educación

repago farmacéutico reducción o congelación del sueldo de los funcionarios recortes en las pensiones reformas laborales contra los trabajadores

y la exclusión social y corrupción corrupción institucionalizada corrupción dentro del partido popular una corrupción que supone nada más y nada menos

millónes de euros para las arcas públicas según un estudio recientemente publicado

bajo aquí a defender mis planteamientos con el ánimo al menos de que escuche el proponente qué es lo que digo en lugar de que esté hablando con el compañero de al lado usted se quejaba hace algunos meses de que el resto de grupos no quiso discutir ni debatir con usted una propuesta concreta yo sí bajé

porque no contestó a nada de lo que un servidor dijo y ahora en lugar de escuchar

de lo que le está diciendo este parlamento se dedica a hablar con su compañero usted ha escuchado al resto de grupos ha escuchado ha tomado nota no le extraña que toda la cámara se haya posicionado de manera tan contundente con su idea y con su propuesta

hayamos hablado de cinismo de hipocresía de demagogia de populismo de antipolítica de electoralismo barato de desfachatez o de desvergüenza no le hace a usted esto pensar debería porque la política no se basa únicamente

lanzar cuatro soflamas y sentarse otra vez al escaño intentando que las encuestas mejoren la política no es eso la política también es escuchar

y decir la verdad y lo suyo ya digo que es demagogia y populismo y electoralismo electoralismo barato porque a usted no le interesa ni le importa el fraude

le da absolutamente igual únicamente pretende utilizar

para conseguir un puñado de votos a través de iniciativas absolutamente demagógicas y que no resuelven absolutamente nada ya digo estos son los hechos

recortes en todos los ámbitos de la política y corrupción esa es la realidad sus políticas han sido las que han provocado la exclusión social las que han provocado un incremento de la desigualdad los que han provocado un incremento de la precariedad laboral

sus políticas las políticas del partido popular y en lo que se refiere al sistema vasco de protección social propuestas pero propuestas para recortarlo

falso sus propuestas han sido y van únicamente en la dirección

de recortarlo no para ampliarlo no para fortalecerlo ya digo ni siquiera medidas de lucha contra el fraude en las ayudas sociales únicamente propuestas

inmigrantes y a las personas que peor lo están pasando

ya se lo han dicho si quiere ayudar o si quiere incrementar las pensiones de los pensionistas hable con el gobierno de españa y con el señor rajoy para que tome medidas

han hecho justo lo contrario y la conclusión evidentemente señor maroto como no podía ser de otra manera porque somos ciudadanos adultos es que a usted no le cree absolutamente nadie y por eso recibe las críticas contundentes que recibe

porque no tiene ninguna credibilidad porque se le nota mucho y se nota cuál es su único objetivo hacer demagogia y hacer populismo

está representada en este parlamento la gente de la calle que usted permanentemente cita está representada

y este parlamento le vuelve usted a decir hoy otra vez que no que no está de acuerdo con sus planteamientos con su demagogia y con su

son los recortes es la impunidad y es la demagogia en fin señor maroto

un diez en demagogia y en populismo esa es su nota eskerrik asko maneiro jauna

eskerrik asko berriro señor maroto en este segundo turno se ha quitado usted la careta

el hilo conductor de su discurso en la primera intervención pero sobre todo en la segunda en ningún momento ha nombrado usted al colectivo que dice que quiere defender bueno sí perdón ha nombrado alguna madre

lo reciben en este caso las madres como dice usted es un colectivo mucho más amplio pero usted ha llevado el debate donde quería y creo por eso

desde dónde quería ir y hasta dónde quería llegar pero cómo pretende que le otorguemos credibilidad a su propuesta

a su propuesta cómo pretende que le creamos cuando ustedes están haciendo lo contrario a lo que dicen este es un debate de principio a fin electoralista y hemos debatido con usted pero vamos a votar en contra como le he dicho antes vamos a ver

señor maroto la renta de garantía de ingresos en base a qué se calcula al salario mínimo interprofesional ya sabe usted dónde tiene que empezar a trabajar

la renta de garantía de ingresos seiscientos diecinueve

para un complemento de pensiones setecientos tres coma setenta y tres si ustedes no hubieran propiciado el recorte

ahora ese colectivo al que usted dice defender hoy en día estarían cobrando setecientos setenta euros y están cobrando setecientos tres

ahí su careta de nuevo descubierta eso sí que es demagogia eso sí que es

ustedes quieren poner una tirita minúscula a un colectivo que se desangra se desangra por una herida que han causado ustedes eso es lo que quieren hacer y mezclan la pobreza energética con esto

la pobreza energética para paliar de alguna manera la pobreza energética existen las ayudas de emergencia social ahí entran los gastos subvencionables

por las ayudas de emergencia social sabe usted que para calcular las ayudas de emergencia social la rgi computa como ingreso sabe usted

seguro que no seguro que ni se ha molestado en leerlo ya está bien dejen de hacer campaña electoral ya vale se están aprovechando de un colectivo vulnerable de un colectivo que lo está pasando realmente mal para conseguir un sillón
eso es feo es ruin es penoso ahora aquí queda claro quienes son los jetas eskerrik asko

señor maroto el pleno de control es mañana por lo que no entendemos que se haya dedicado a interpelar al consejero toña y a ponerle nota cuando ni ha intervenido

las veces que quiera en los plenos de control correspondientes qué triste

y todos absolutamente todos los grupos se pronuncien con calificativos tan duros como discurso vacío carente de credibilidad pura demagogia populista zinikoa hipokrita xenofoboa desfachatez electoralismo barato

coinciden algo tendrá de cierto verdad de tramposo le han tildado y qué quiere que le diga ha quedado claro que de las palabras a los hechos hay un gran trecho y ustedes dicen

la contraria prueba del algodón se ha referido a la prueba del algodón un montón de veces y además refiriéndose al consejero toña

ustedes el partido popular sí que tienen la posibilidad de subir las míseras pensiones a las que ha hecho referencia durante su intervención tienen los mecanismos

dejen a un lado la demagogia y dejen de poner deberes para el resto de administraciones y solucionen el grave problema de las bajísimas pensiones de los y las pensionistas ahí tiene su prueba del algodón bien clarita

hablando del fraude ha mencionado a los argelinos que bueno como le decía la señora blanco por fin se ha quitado la cartea y ha ido a lo que

como estamos en época de carnavales parece que usted se ha adelantado un poco y viene con la piel de cordero como le decían y habla de dinero que usted no quiere incrementar el dinero sino que ese dinero del presunto fraude que se utilice también

que es el dinero del depósito de tormentas de yurre que son

también desde el ayuntamiento lo podría haber dedicado a la rgi pero

para otros menesteres el partido socialista el señor pastor decía que
la ley habría que abordarla las modificaciones isiltasuna mesedez con el mismo espíritu con el que se puso en marcha

habría que hacerlo con el mismo espíritu y con el amplio consenso que se consiguió cuando fue aprobada dicha ley compartimos ello por eso no vamos a aprobar tampoco su enmienda porque creemos que lo único que hace
es el caldo gordo al señor maroto isiltasuna mesedez

con la de upyd creemos que ha quedado medianamente claro que el señor maroto quería una cosa

cincuenta euros a los y las pensionistas pero allí donde pueden y deben incrementar las pensiones no hacen absolutamente nada e intentan poner deberes a los demás insisto hagan y sean valientes

míseras pensiones de los y las pensionistas allí donde corresponde que es en madrid besterik ez mila esker eskerrik asko arregi andrea eztabaida amaitu denez

egun on guztioi bueno este es un tema

no es la primera vez que se trata en este parlamento lo hemos traído otra vez porque ante todo

los planes del ministerio de fomento al menos anunciados el mes pasado por la

planes que perjudican a una población machacada tradicionalmente la de la zona minera que tiene sus núcleos poblacionales

por todo tipo de trenes por todo tipo de mercancías por un urbanismo que es preciso regenerar y en ese contexto nosotros hemos defendido siempre dos cosas fundamentalmente para

no atraviesen núcleos urbanos bajo ningún concepto y para ello para dar una solución definitiva

y al tramo que va desde barakaldo hasta basauri pasando por bilbao que se active el proyecto de la variante sur ferroviaria esos dos aspectos son irrenunciables para el partido socialista tanto aquí

de la zona defendemos lo mismo nosotros sí aquí

y esto lo defendimos hace un año en este parlamento en comisión y salió adelante una propuesta del partido nacionalista vasco porque

faltó en la votación un parlamentario del grupo socialista si no hubieran decaído por el tipo de votación todas las enmiendas quiero decir

del parlamento que no es una decisión tomada por el pleno de la comisión sino por una circunstancia que tiene su importancia por la división de posturas que hay en este tema precisamente por esto registramos la pnl a finales del año pasado y las declaraciones de la ministra del pasado noviembre

activar la infraestructura y cito textualmente y después ver alternativas para la circulación externa se entiende de los núcleos poblacionales

abrir o ver estudiar alternativas para la circulación externa a partir de ese momento con lo cual el problema que queremos evitar era ineludible

a mediados del pasado mes es decir hablamos de enero ya de este año la plataforma meatza moviliza cerca de dos mil vecinos de ortuella

trapagaran y protestan porque durante tres meses dicen el gobierno vasco no les da una respuesta concreta la semana pasada el viceconsejero de transporte se explica a los alcaldes según dicen de santurtzi

una propuesta que dice ya ha trasladado el gobierno al ministerio de fomento pues bien como el punto era el día de hoy y aquí

buscando un acuerdo que solucione el problema para los vecinos para tener la información llamo a la consejera de transportes que está aquí presente hace dos días a las nueve cero de la mañana he solicitado a finales del mes pasado la información

del proyecto que el gobierno vasco ha presentado a fomento tiene un plazo para responder cuando lo responda lo veremos pero yo llamé a la consejera para pedirle por lo menos una explicación más o menos detallada

para apoyar si fuera necesario la consejera me indica que a lo largo del día tendré una respuesta esto era el martes a las nueve cero de la mañana

no se había producido esa información no había llegado y no hablo de un proyecto detallado hablo de una explicación

si es que hay alguna novedad de verdad que me huelo que no entonces este asunto llaman del grupo parlamentario y una

dice que la consejera no se puede poner y que el viceconsejero está liado y hasta hoy es decir que este parlamentario ante esta iniciativa quiere comentar con el gobierno lo que públicamente esta declarando y dice que ha hablado con los alcaldes de la zona y no hay respuesta yo se la demandé personalmente a la consejera en fin a pesar de eso

parlamentario del partido nacionalista vasco que lleva este tema para ofrecerle una transacción una transacción en la cual yo asumo

los dos puntos de la enmienda del grupo nacionalistas vascos que se refieren a la variante sur ferroviaria de acuerdo

un añadido que ya propuse hace un año al representante en aquel momento era otro también del partido nacionalista vasco y es

o que el parlamento vasco rechace firmemente el paso de mercancías procedentes del puerto de bilbao por núcleos urbanos de la línea dos de cercanías

a bilbao solo eso es decir lo que se dice de palabra lo que se está diciendo en la zona que conste

en la decisión de este parlamento que este parlamento rechaza que se atraviesen los núcleos poblacionales sigo sin entender sigo sin entender por qué algo que se vende constantemente en ortuella en trapagaran

eso no se puede poner en el papel rechazar firmemente el paso por los núcleos poblacionales de

de toda la línea dos de cercanías de renfe de muskiz a bilbao rechazar

de las mercancías no entiendo por qué en cualquier caso estamos entonces con una propuesta que por desgracia

su interés en este asunto y aquí hoy lo deja claro

lo que también queda claro es que la noticia de prensa de que el gobierno vasco ha propuesto a fomento un proyecto

no tiene ninguna consistencia no entiendo si no por qué el departamento

unas notas de en qué consiste sí que han mandado y lo he visto ayer por la tarde

un par de alternativas que no son más

que tratan de llevar

el plano es muy pequeñito de llevar hasta la acería de sestao la salida de

claro tienen que atravesar una autovía tienen una serie de problemas técnicos que hace diez años hicieron desechar ese asunto

no tenemos en cualquier caso nada para discutir hoy concreto no tenemos nada

hubiera estado bien una explicación a los grupos para el día de hoy

de transportes para explicar claramente si de verdad hubiera una alternativa y en cualquier caso lo que ha propuesto lo ha aceptado

como proyecto o lo va a analizar evita el paso por los núcleos poblacionales o pasa por algún barrio porque estoy seguro de que sí y en cualquier caso si no apostamos por reactivar la variante sur ferroviaria cualquier solución que se considere más o menos razonable por algún grupo

a barakaldo al abrir el túnel el tráfico de mercancías aumentará desde el puerto lógicamente

en el cuello de botella de olabeaga se va a colapsar en la entrada de bilbao porque

para doblar hacia la casilla tienen que ocupar las dos vías

o a colapsar sí o sí con la apertura del túnel si no hay una solución que sea la de la variante sur hay problemas que hay que abordar antes de abrir ese túnel y es tener en cuenta los núcleos poblacionales que no pasen

por ahí porque son trenes largos de gran envergadura con transporte peligroso más lentos

eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta las necesidades de regeneración urbanística de toda la zona

que los ayuntamientos de bilbao de barakaldo están trabajando

en el desarrollo urbanístico en las zonas conjuntas y concretamente por ejemplo en una zona de bilbao

va a ser una expansión de bilbao la última grande integral en la que va a haber un tipo de industria moderna viviendas de protección oficial y un gran desarrollo urbanístico

a aumentar el paso de trenes de mercancías cortando además

rompiendo el urbanismo de esa zona y pasando al lado de las nuevas casas un flujo mayor

en fin como no hay ningún compromiso claro

sin aceptar que el paso por los núcleos poblacionales de trenes de mercancías se evite para evitar más perjuicios a la población

y no podemos lógicamente acordar con el partido nacionalista vasco también lo he intentado con la señora

unas posiciones que son claras y hace un planteamiento

sin garantizar loactual que no podemos lógicamente entrar al acuerdo concreto de solucionar el problema real en cuanto al señor maneiro de upyd habla también de cosas que están bien como impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril a través de la adaptación a las necesidades del mercado y criterios de eficiencia que están bien pero

no se corresponden con el tema exactamente que discutimos hoy del túnel de serantes por lo tanto a la espera de

gracias presidenta el túnel del serantes

de bizkaia costó cincuenta millónes de euros y se excavó un lustro entre dos mil cinco y dos mil nueve el motivo de que una infraestructura de este calado carezca por el momento de utilidad alguna

una línea para trenes de mercancías que se diseñó pensando en unir el túnel con basauri a lo largo de dieciocho kilómetros una obra colosal

a los seiscientos millónes de euros según datos de hace algunos años la idea de horadar el serantes y buscar una salida directa a los trenes con contenedores y mercancías incluidas las peligrosas que atraviesan actualmente el casco urbano de santurtzi

hace dos décadas en el año dos mil señor cascos llegó al ministerio de fomento y dio el impulso definitivo al túnel cuentan que del pp se llevó una sorpresa mayúscula cuando descubrió que más del noventa por ciento de las cargas portuarias salían o entraban

por carretera el plan que le presentaron los ingenieros le pareció brillante pasaba por excavar tres coma seis kilómetros de corredor subterráneo

al otro lado del macizo costero allí enlazaría con la ce dos la red de cercanías que une muskiz y barakaldo que debería ser totalmente remozada para

y pesados durante los trabajos de ejecución del túnel se llegó al acuerdo interinstitucional con la participación de diferentes organizaciones sociales de que este solo entraría en pleno funcionamiento cuando la variante sur ferroviaria fuese una realidad con la posibilidad de que en caso de ser estrictamente necesario

para dar salida a las mercancías del puerto de bilbao a través de ortuella y trapagarán el pasado dieciséis de octubre conocimos por los medios de comunicación que durante una reunión con la señora quiroga la ministra de fomento la señora pastor

urgente solución que pasaría por su inmediata puesta en funcionamiento para que los trenes de mercancías comiencen a salir del puerto de bilbao a través de la línea dos de cercanías renfe abriendo así la puerta a una supuesta ampliación del parque de santurtzi tal y como viene reclamando el alcalde de esa localidad en definitiva es un conflicto un conflicto complicado además de resolver entre los municipios de trápaga y ortuella frente al de santurtz i y

cincuenta millónes de euros y que pueden ir a la basura ya que no parece muy probable que la variante sur ferroviaria se vaya a realizar de manera inminente o incluso

porque nos parece interesante cuáles son los efectos de que el noventa por ciento de las mercancías vayan por carretera y son los siguientes pérdida de competitividad del tejido productivo

en el que la importancia de los costes logísticos es crítica al alargarse las cadenas intermodales y especialmente en nuestro país debido a su situación periférica dentro de la unión europea importantes costes

ambiental por el uso masivo del modo carretera incremento de la dependencia energética de combustibles fósiles derivada de la baja utilización del sistema ferroviario sistemática degradación de la colaboración entre los modos de transportes costes de la no actuación por los impactos generados en la baja sostenibilidad del sistema de transportes entre otros siendo conscientes de que la apertura del túnel genera polémica

y trápaga creo que el ministerio tiene tenía razón a la hora de proponer la apertura del túnel

del puerto de bilbao además de rentabilizar la inversión de cincuenta millónes de euros mientras que quedar a la espera de la variante sur ferroviaria en nuestra opinión en fin es un brindis al sol y estas consideraciones y estos argumentos se han visto enturbiados por el proceso preelectoral

entre el ministerio de fomento el puerto de bilbao el gobierno de euskadi y los municipios implicados sobre el proyecto de la variante sur ferroviaria que permita dar salida al tráfico de mercancías desde el puerto vasco uno de los mayores anhelos de la autoridad portuaria veremos en todo caso nosotros en qué queda esa idea y en qué queda ese proyecto y por otro lado el viceconsejero de transportes se reunió el día cinco de este mes con los alcaldes de santurtzi

al ministerio de fomento sobre la mejora de las conexiones ferroviarias del puerto de bilbao y la propuesta formulada al ministerio para realizar un túnel en doble vía desde serantes a la acb evitando santurtzi y lo núcleos de ortuella y trápaga a modo de conclusión

como tantas veces ha ocurrido en este querido país el pp al parecer como es año electoral en fin parece que no se acuerda de la propuesta de la ministra de abrir el túnel

y qué es exactamente lo que defiende y por otro lado el partido nacionalista vasco ha encontrado al parecer una solución milagrosa haciendo una especia de filigrana desdoblando el túnel y conectándolo con la acb gran obra no prevista no presupuestada

muy cara y que además no concreta en definitiva se han tirado cincuenta millónes de euros no se ha solucionado el problema del tráfico de mercancías del puerto y ahora para evitar tomar una decisión estratégica y necesaria debido a la presión

de tres municipios se hace y se propone un brindis al sol en aras a un hipotético acuerdo interinstitucional que con toda seguridad saldrá muy caro en definitiva por todo ello y reconociendo que las soluciones no son fáciles

defender nuestra enmienda de totalidad en la que proponemos que este parlamento inste al gobierno de españa a impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril a través de la adaptación

con objetivos de mejora de la gestión del sistema de la calidad de servicio de la eficiencia y de la sostenibilidad y proponemos instar al gobierno de españa

con criterios de eficiencia para evitar que se repita

expansiva de la burbuja de infraestructuras que hemos padecido en españa y que solo ha generado despilfarro paro y corrupción por todo ello nosotros
vamos a votar a favor de nuestra enmienda de totalidad gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

egun on guztioi hoy nos trae el grupo socialista

siendo aprobada la enmienda presentada por euzko abertzaleak usted señor reyes presenta hoy para su aprobación nuevamente

y le recuerdo que en esa comisión se adoptó un mandato parlamentario plenamente válido a pesar de sus circunstancias como reconocido

el cual todo hay que decirlo y como luego pondremos de manifiesto antes de ese mandato ya estaba trabajando en el tema y es cierto que desde entonces ha habido cambios al respecto

nuestra propuesta básicamente decía y dice en primer lugar que se inste al ministerio de fomento a continuar con el desarrollo

dando continuidad al túnel de serantes y en segundo lugar que se inste a la administración general del estado y al gobierno vasco

ofreciendo la posibilidad de la fórmula de un convenio entre ambas administraciones para llevarlo a efecto a nuestro juicio la construcción de la variante sur ferroviaria de la que el túnel de serantes es solo una parte solamente una parte

irrenunciables en primer lugar contribuiría de forma notable al incremento del tráfico ferroviario con origen y destino en el puerto de bilbao

en el desarrollo de la actividad económica vasca simplemente dar los datos del dos mil catorce en los cuales se ha dado un incremento del cuatro por ciento con respecto a dos mil trece en el cual el catorce por ciento de los

se han transportado por ferrocarril y ese catorce por ciento una quinta parte el diecinueve por ciento son contenedores

con un total de casi cuatro mil trenes lo que supone

por otro lado cualquier solución de la conexión ferroviaria debe pasar por cumplir el compromiso del ministerio en el año dos mil siete recuerdo gobierno socialista de suprimir los tráficos ferroviarios de mercancías por el municipio de santurtzi

de cercanías que discurre por los municipios de ortuella y trapagarán y estos requisitos se cumplen desarrollando una primera fase del proyecto de la variante sur ferroviaria cuyo estudio informativo se formuló en dos mil ocho y que tras el periodo de información pública se quedó en un cajón durmiendo

en túnel de doble vía que conecte desde el túnel de serantes hasta la acb sin atravesar santurtzi y sin afectar a los núcleos urbanos de ortuella y trapagarán ni a su línea de cercanías el ministerio de fomento

de este proyecto en el menor plazo posible por lo tanto es evidente que partimos de un punto de vista radicalmente distinto al del grupo socialista y por lo manifestado también al

firmemente la puesta en funcionamiento bajo ningún concepto del túnel de serantes nuestro planteamiento es en positivo continúese con el desarrollo del proyecto de la variante sur ferroviaria

con el planteamiento socialista qué se consigue nada seguir igual dejar el estudio informativo del dos mil ocho en el mismo cajón

al túnel con nuestro planteamiento se consiguen varios objetivos en primer lugar mejorar y garantizar el tráfico ferroportuario y mejorar los datos que he facilitado anteriormente

facilitar el cumplimiento del compromiso del gobierno español socialista del dos mil siete con el ayuntamiento de santurtzi para liberar los tráficos ferroviarios de mercancías de su municipio y destinar esos suelos al uso público cómo piensan si no cumplir este compromiso el grupo socialista simplemente con no abrir el túnel

no se puede conseguir en tercer lugar no afectar al tráfico de pasajeros en cuarto lugar evitar que se incorporen tráficos de mercancías

de cercanías que discurre por los municipios de ortuella y trapagarán y en último lugar dar utilidad social y rentabilidad a los más de cincuenta millónes de euros invertidos por el gobierno socialista

su apertura usted señor reyes tiene costumbre de hablar de pájaros y flores etcétera y en este tema vamos a hablar de hechos de datos concretos nosotros el partido nacionalista vasco ya en el programa electoral hacía referencia a este punto y decía

y visto que no se encontraba entre las prioridades del ministerio de fomento ofrecía esa posibilidad de vía encomienda realizar las obras

antes del mandato parlamentario de diciembre de dos mil trece la consejera remitió una carta a la titular

a colaborar en el avance y desarrollo del proyecto de la variante sur ferroviaria y planteándole la posibilidad de suscribir un convenio utilizando la vía del concierto económico la ley del concierto económico

si quiere luego le puedo dar más datos concretos de reuniones cartas y demás

sobre este tema tampoco no tenemos conocimiento datos señor reyes no palabras que los responsables

y respecto al proyecto de la variante sur ferroviaria no sé si no lo conoce o le he interpretado mal lógicamente

ese objetivo otro dato que nos llama la atención sobremanera de su pnl

quizás eso pueda explicar que durante el mandato socialista en dicha institución poco o nada se hizo al respecto en este tema que tanto les preocupa quizás pensaban que el gobierno vasco poco tenía que hacer en este tema

respecto a la transaccional sí es cierto y valoramos su intención de llegar a un acuerdo pero como le dije nosotros habíamos

una enmienda transaccional en la comisión de diciembre y las cosas se están haciendo

que esa es la vía a seguir y no introducir ninguna otra cosa que modifique porque no hay motivo para modificar

comentaba que llamó a la señora consejera esta semana para pedirla información yo le recuerdo que usted solicitó información documentada

y que el plazo para contestar es hasta el tres de marzo sin recurrir a ningún amparo de la mesa la junta de portavoces que fijó este pleno fue el cinco de febrero decía usted

que no tenemos nada que discutir hoy señor reyes quién ha incluido el tema en el orden del día del pleno de hoy sin tener la información nosotros no nosotros no

sí que observamos algún cambio aunque creemos que no de fondo sino formal tal y como ha quedado de manifiesto con

ya que en diciembre de dos mil trece planteaban los dos puntos que recoge su enmienda de totalidad actual más otros dos puntos que completan y dan la visión clara de su planteamiento sobre este tema

y en segundo lugar que se declare inviable y se abandone también el proyecto de la variante sur ferroviaria

en su forma de proceder está dentro de su línea de oposición a todo por otro lado solicitan que se abra un debate social sobre la organización del territorio de los modelos de transporte y en este sentido hemos de decirle que llevamos más de treinta años debatiendo y trabajando en esta materia y ustedes ni estaban

a algunos de ustedes sí ya que a comienzos del milenio se empezó a redactar

sí aquel gobierno tripartito formado por el pnv eusko alkartasuna y ezker batua

pregunte en este mundo mutante algunos compañeros de bancada y en su coalición sobre dicho debate y su posicionamiento al respecto

en el dos mil cinco y dos mil siete por lo tanto entendemos que el debate igual lo tienen que hacer dentro de su propia casa para aclararse

pues bueno no sé si se refería a este o a otros en concreto aquí lo que se trata es de buscar alternativas factibles para solucionar la problemática entonces qué es lo que pretenden creemos queremos creer que no pretenden cerrar el puerto de bilbao ni su actividad económica

en ocasiones aquí en esta cámara se han mostrado partidarios de apoyar el transporte por ferrocarril de trasladar

descongestiona la carretera reduciendo la contaminación por ce o dos cuál es su propuesta para resolver su problemática de la entrada y salida

le han comentado aquí nos parece bien como declaración de principios pero no soluciona nada de la problemática lo mismo sirve para el túnel de serantes variante sur ferroviaria que para el ferrocarril de murcia

que permitan un crecimiento económico del puerto de bilbao en línea con el primer apartado de su enmienda

establece la conexión transeuropea ferroviaria bilbao como prioritaria y precisamente a iniciativa de la comisión europea en este caso ni del gobierno español

por tanto entendemos que nuestra enmienda es la que mejor puede resolver este problema y votaremos en contra de la de upyd finalmente respecto al partido popular

en esta ocasión y a fuerza de ser justos hay que reconocer que desde hace algunos meses

por el gobierno vasco en la materia que ahora tratamos como he puesto de manifiesto anteriormente y es por ello que queremos finalizar agradeciendo el apoyo del grupo popular a nuestra enmienda a la totalidad creemos que nos van a apoyar

predisposición del ministerio de fomento para buscar la colaboración con el gobierno vasco amaitu bigarren buelta